tal y como este parlamento ha denunciado y condenado la homosexualidad está perseguida en setenta y seis países y castigada con pena de muerte en arabia saudí irán yemen mauritania sudán afganistán y algunos estados de somalia y nigeria recientemente se ha sumado a esta ignominiosa lista en europa rusia

persiguiendo incluso su derecho de manifestación y de libertad de expresión en áfrica

y los defensores de los derechos humanos de las personas les

con especial virulencia en nigeria uganda

está en manos de toda la sociedad y también de los representantes de la ciudadanía la responsabilidad última de promover los cambios sociales precisos para que estos colectivos puedan vivir

bi el parlamento vasco asume como propio el objetivo de poner fin a la violencia y la discriminación contra las personas

por ello denunciamos como inaceptable que la asamblea general de naciones unidas vaya a estar presidida a partir de septiembre a propuesta de los países africanos por el ministro de exteriores de uganda sam kutesa

a las personas homosexuales y persigue sistemáticamente a los defensores de los derechos humanos

hobetzen joango ginela dos mil trece y dos mil catorce serán años muy difíciles en dos mil quince se prevé que mejorará la situación

tanto desde que ostenta el cargo como incluso antes en la campaña electoral en la que usted una y mil veces lo repetía los dos primeros años serán francamente complejos a partir de dos mil quince esperamos remontar eta badirudi aurrikuspenak beteko direla aurreko astean

handitzea espero da según los datos del cuadro macroeconómico que nos han presentado desde el gobierno vasco

y un aumento del nivel de empleo del cero coma seis por ciento informazio hau entzun ondoren

atzeralditik garapenera el programa marco por el empleo y la reactivación económica aprobado por el gobierno vasco y apoyado en los acuerdos alcanzados

las expectativas son positivas porque los indicadores también lo son el acceso al crédito se ha activado se ha recuperado la inversión hemos ganado en solvencia

y las exportaciones crecen el último dato positivo es que el consumo crece

un uno por ciento en el último interanual y un dato más de ayer la demanda interna se ha situado en positivo

seguidos en negativo la economía vasca está creciendo por tercer trimestre consecutivo después de dos años y medio de recesión y lo que es más importante

signo positivo en lanbide que logró reducir el número de personas inscritas en el paro esa tendencia positiva del empleo se va a mantener también en junio

se va a incrementar la población ocupada esperamos poder reducir el paro registrado

además en dos mil quince creceremos en uno coma siete por ciento y crearemos empleo neto

la estrategia de apoyo a la empresa y la concertación están dando sus frutos el crecimiento es moderado pero continuo desde la prudencia
tenemos confianza en que vamos a seguir creciendo y ofreciendo nuevas oportunidades de empleo en euskadi eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

pero lo que tenemos aquí es un posible caso de malversación de fondos porque la malversación de fondos exactamente destinar a usos ajenos de la función pública los dinero públicos

no es una función pública hacer propaganda de tres departamentos de una manera indirecta con dinero público sin decir que se está pagando

por parte de tres departamentos del departamento de educación del departamento de empleo

aquí se ha hecho un fraude sobre todo a la confianza de la ciudadanía y esto es muy grave porque cómo se recupera la confianza cómo se le dice a la ciudadanía que lo que se ha estado haciendo mal ahora se va a hacer bien que se han pagado casi

dedinero público para hacer una propaganda camuflada de tres departamentos

esos artículos que esos reportajes estaban pagados y que se estaba haciendo un uso fraudulento de los dineros públicos de eso es lo que estamos hablando camúflelo como quiera camúflelo

que se ha utilizado dinero público para hacer una propaganda camuflada de una manera

aparte de un nombre legal como puede ser malversación de fondos supone favoritismo supone enchufismo y supone amiguismo eso es lo que estamos viendo aquí por lo tanto el tema es esto es

azken bolada honetan izan da en gipuzkoa hacemos las cosas bien españa va bien haren

señor lehendakari artículo cinco punto tres de la ley de publicidad y comunicación institucional la publicidad institucional no debe conducir a errores

o cualquier otra circunstancia sé que el pnv no votó esta ley se abstuvo como tenía por costumbre en las iniciativas del anterior gobierno así que le cito también un texto de su propio ejecutivo

la honestidad en el ejercicio del cargo público implica además ser capaz de transmitir veracidad credibilidad y no recurrir al engaño o a la distracción o al encubrimiento

los miembros de su gobierno dan dinero de todos los ciudadanos a un grupo de noticias concreto afín a su propio gobierno y a su propio partido

porque con dinero de todos enmascara la pura propaganda como si fueran noticias reales engañan a los lectores

lo hacen de forma reiterada desde varios departamentos y el beneficiario es siempre

por eso le preguntamos cuál es su criterio ante la reiterada compra de espacios de noticias para realizar publicidad encubierta vulnerando la ley de publicidad
y de comunicación institucional y también el código ético de su gobierno eskerrik asko pastor jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

austero y escrupuloso en la administración de los recursos públicos destinados a la publicidad ambas cosas austero y escrupuloso austero porque el año dos mil trece cuya memoria está hoy en el parlamento a disposición de todos los parlamentarios dedicó a publicidad exactamente la mitad del dinero que como media anual dedicó el gobierno anterior desde entrada en vigor de la ley de la que estamos hablando no se pongan nerviosos permítanme concluir

el año dos mil doce ocho coma seis millónes de euros el año dos mil trece este gobierno cuatro coma ocho millónes de euros la mitad de la media

está siendo escrupuloso también en el reparto de los espacios hecho referencia antes se ha ajustado rigurosamente a la

en la prensa escrita sin ir más lejos como aparece en la memoria vocento se llevó el diecisiete por ciento noticias el siete coma siete por ciento gara el dos por ciento un poco menos el país uno coma tres por ciento berria uno coma uno por ciento y el mundo uno por ciento una correspondencia por tanto puntual escrupulosa entre los listados del cies y el reparto de publicidad

por lo que se refiere a la distinción entre campañas y patrocinios acabo de hacer una breve referencia a la misma cuestión a la señora mintegi que aunque haya sido en euskera supongo que usted la habrá comprendido que

por reglas absolutamente diferentes en esta materia por tanto legalidad

absolutamente incontestable por tanto por parte del gobierno por cierto el patrocinio se ha repartido escrupulosamente también en función de las solicitudes de los medios de comunicación

que han recibido patrocinio que han sido patrocinados en algunas de sus iniciativas publicitarias por parte del gobierno y no tienen

mire primero lamento de verdad que el lehendakari no haya querido dar la cara y haya preferido parapetarse tras su portavoz y sinceramente señor erkoreka

porque es absolutamente incomprensible porque yo no lo estoy discutiendo cuánto se gasta

y cómo se hace y usted está usted su gobierno están engañando a la ciudadanía dando por buenas publicidades y propagandas que se venden como noticias

par todas las empresas de euskomedia promoción de turismo vasco difusión y actividades propias del departamento de empleo congreso de programación profesional

al margen de inserciones publicitarias a doble página mi grupo le preguntó por escrito al respecto y usted se limitó a decir que es algo que deciden los departamentos contestación del lehendakari y no se conformó en dos mil catorce llevan ya cincuenta y cinco mil euros al menos que sepamos para difundir la actividad del departamento de salud

esto no es un debate sobre gasto en publicidad porque la pasada legislatura de la que no estamos hablando por cierto aunque a ustedes les gusta recurrir como al pp a la herencia recibida

pero el problema no es lo que se gasta sino qué es lo que se quiere hacer con ese supuesto gasto en publicidad y si ustedes camuflan

determinadas partidas y además se las adjudican a un grupo y engañan a la población porque en ningún momento se indica que esas informaciones sean gastos de publicidad sino que se dan como noticias veraces ustedes están incumpliendo la ley de publicidad y están incumpliendo también su propio código ético

sobre todo señor erkoreka sobre transparencia un debate sobre control de los recursos públicos y un debate sobre la utilización de esos recursos para favorecer a medios afines

y por eso yo le quiero pedir al señor lehendakari como responsable máximo de este gobierno

responsables de este desaguisado y por supuesto le pido también que recupere ese dinero público que jamás debió salir de las arcas públicas para estos términos eskerrik asko

señor pastor mi actitud y mi posición será incomprensible lo que es incomprensible es su actitud planteando estas preguntas después de lo que ustedes tienen por detrás mire vamos a ver usted me está hablando solamente

todos los patrocinios que han sido objeto de materialización por parte

van a tener a su disposición en este parlamento pero le voy a poner unos ejemplos de que

incompleta y por tanto falsa eso sí que es falsear la realidad fíjese patrocinios del año dos mil trece

por ochenta aniversario de radio bilbao seis mil euros a onda cero por un programa sobre euskadi como destino turístico y de inversiones ciento cincuenta mil euros al correo por fun and serious game un programa que no no

usted cree de verdad que todos estos medios de comunicación son afines a este gobierno lo dice en serio no digo del anterior de este gobierno usted cree de verdad que todos estos medios de comunicación en el contexto del patrocinio aprovechan este dinero para aplaudir gratuitamente este gobierno no no diga toda la verdad

isiltasuna mesedez no haga una selección sesgada de los casos

públicas y el patrocinio está seleccionado equitativamente con todos los grupos si quiere

zurea da hitza gracias señora presidenta buenos días a todos buenos días lehendakari

como hoy ha dicho aquí adelantándose a mi pregunta el pasado diecisiete

y a su vez y en consonancia con las mismas realizaba las previsiones en materia de creación de empleo anunciaba así un crecimiento del pib de uno coma siete que usted hoy aquí ha reiterado y la creación de cinco mil empleos netos

que para octubre podría presentar incluso unas previsiones aún mejoradas a tenor de los parámetros económicos que ustedes manejaban

que desde el partido popular mostramos nuestra satisfacción por la mejora de las previsiones económicas y por los datos de empleo pero no es menos cierto que esas previsiones nos generan muchísimas dudas este grupo parlamentario está dispuesto a arrimar el hombro y a contribuir

porque esa debe ser la principal preocupación de su gobierno señor urkullu

vascos que siguen en las listas de lanbide a la espera de poder incorporarse al mercado laboral y no queremos que ustedes generen

porque serían injustas para todos aquellos vascos que esperen su oportunidad y tampoco queremos que se apropien en exclusiva del crecimiento porque sería falso que la economía vasca

por todo ello rogamos que nos explique si los parámetros que ustedes están utilizando para dar los datos de crecimiento el pib y de creación de empleo el dos mil quince son
de responsabilidad de su gobierno cree que es mérito exclusivamente suyo eskerrik asko llanos andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

en las directrices económicas en las directrices para la elaboración del anteproyecto de presupuestos mire le voy a volver a indicar o le voy a volver a destacar diez indicadores

los servicios también crecerán el uno coma seis por ciento la construcción frenará su deterioro acercándose a la estabilidad la demanda interna aumentará el uno coma cinco por ciento y la externa el cero coma dos por ciento

hogares mejora gracias al aumento de la confianza de los consumidores y a los bajos tipos de interés la evolución del entorno internacional es positiva con un crecimiento previsto por el fmi del tres coma nueve por ciento la zona euro recupera también el dinamismo con un crecimiento del uno coma cinco por ciento crece la inversión en construcción

aumenta la cuota vasca de comercio y crecen las exportaciones en este momento del tres coma cuatro por ciento la política económica del gobierno vasco también es seria y es rigurosa y este también es un indicador uno más de entre todos los indicadores

y los condicionantes con los que ha contado este gobierno para la elaboración de las previsiones sobre creación de empleo y crecimiento económico

ya ha comenzado y la previsión es que en el año dos mil quince el crecimiento del uno coma siete por ciento suponga por primera vez desde el inicio de la crisis la generación de empleo neto

a tiempo completo y en relación a lo qué es la apropiación o no apropiación creo que en la pregunta anterior de la señora gorospe

a los criterios también de concertación que aplaudo y que seguiré impulsando eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna llanos andrea zurea da hitza

gracias señora presidenta mire señor lehendakari ya en mi primera intervención le he expresado la voluntad de mi partido para colaborar en todo aquello que ayude a mejorar la economía y a crear empleo pero también le he expresado las dudas

y estas dudas además no son hechas de forma gratuita o arbitraria sino que se sustentan en previsiones pasadas y en el incumplimiento de las mismas ustedes para el ejercicio dos mil trece

doce mil setecientos nuevos puestos de trabajo y los resultados fueron

porque se destruyeron precisamente el número de puestos de trabajo que ustedes habían prometido crear tengo que decirle que si tomamos como referencia los datos de empleo interanuales de mayo

lo que supone un seis coma cinco por ciento en euskadi ese descenso fue solo

somos la comunidad autónoma donde menos se ha reducido el paro en el último año señor urkullu ustedes pretenden trasladar la imagen de que cuando euskadi va mal en términos económicos se debe a que la marca españa lastra

el mérito es exclusivamente suyo pues mire no solamente el entorno internacional en españa las cosas empiezan a ir bastante bastante mejor de hecho la previsión de crecimiento del pib en españa es del dos coma dos por ciento

aquí los crecimientos se han dado en el año dos mil catorce y en el dos mil trece en españa los crecimientos

se están notando como digo con mayor retraso y eso solo tiene un responsable que es la inacción de su gobierno que hace planes pero planes que no dan resultados porque se sustentan en su propia incapacidad

de que muchos vascos puedan acceder al empleo no intenten capitalizar la recuperación económica señor lehendakari esta va a llegar a euskadi no de su mano

por cierto todas ellas rechazadas por el partido nacionalista vasco

y eso ustedes lo votaron en contra ustedes pretenden presentar la economía

que no la economía nacional y la vasca no son entes diferenciados sino vasos comunicantes y españa va a salir de la crisis y gracias a eso

eskerrik asko legebiltzarburu andrea hombre señora llanos siguiendo su razonamiento si

cuando empiecen los datos a ir bien espero que por la misma regla de tres

la capacidad de hacer que las cosas reviertan y que los datos positivos sean también gracias a la acción de este gobierno yo no sé no entiendo cómo en un tema como este usted viene a plantear aquí una confrontación con lo que es la evolución en el conjunto del estado español y la economía vasca es que no acabo de entenderlo cuando lo que

positiva en cualquier caso sí le diré una cosa mire en el año dos mil trece lanbide terminó con menos desempleo que lo que terminó el año dos mil doce y el año dos mil doce ustedes

son más pausados sí pero son más sólidos más seguros

si el mercado español crece y me parece muy bien es positivo para nuestras empresas el problema económico en españa es diferente señora llanos y usted lo sabe perfectamente la caída fue mayor y la situación actual es peor en españa

es más débil es una economía más expuesta a la incertidumbre y a las variables coyunturales en euskadi sin embargo contamos con otro factor de estabilización que lo he dicho antes que son

amplio consenso en materia de estabilidad presupuestaria en políticas de estímulo para la reactivación económica y empleo consenso en materia fiscal y reducción del déficit

ha participado en todos estos consensos esta base consensuada sólida y rigurosa es la que favorece el crecimiento económico sostenible

de esta cuestión aplaudiendo también el consenso alcanzado no sé cuál es el debate

sí gracias presidenta buenos días a todas y a todos en junio del año pasado upyd presentó una iniciativa en el congreso de los diputados con la idea de que
pudiera impulsar todas las reformas legales que fueran necesarias incluidas reformas constitucionales para hacer posible que en españa no hubiera ni un solo aforado

upyd presentó en esta cámara una iniciativa semejante para tratar de instar al gobierno vasco y al gobierno de españa para que impulsara todas las reformas legales que fueran necesarias para

aforamiento todos votaron en contra lo cual demuestra evidentemente que existe digamos una resistencia numantina de los partidos políticos tradicionales de los partidos políticos viejos una resistencia a impulsar

necesita incluyendo la supresión del aforamiento consideramos que es imprescindible preguntar al lehendakari por la anacrónica institución del aforamiento

su mantenimiento su supresión o su reducción

y más de cuatrocientos en euskadi entre los cuales se encuentran los miembros del gobierno parlamentarios ararteko jueces y fiscales entre otros la pregunta que le hago señor lehendakari es partidario usted de ir dando pasos hasta lograr la supresión total de la anacrónica figura del aforamiento y ya de paso señor lehendakari que nos explique también cómo es esto de que usted critique el aforamiento del rey

nadie debe ser aforado pero sin embargo defienda el suyo propio gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

y voté a favor de analizar el aforamiento así lo voté para ello en esta misma cámara como usted ha dicho el pasado día doce hace dos semanas

y sus límites señor maneiro soy partidario de mantener el principio de igualdad ante la ley soy totalmente contrario a la impunidad

confunda intencionadamente aforamiento con impunidad de lo que se puede deducir de este planteamiento en este debate al aforado se le juzga igual pero lo hace un tribunal tenemos ejemplos muy cercanos señor maneiro en este país se ha procesado a un lehendakari

a miembros de la mesa de esta cámara a altos cargos de partidos políticos el aforamiento nunca supone impunidad y esto es lo que debemos dejar claro

de reflexionar de adecuar esta cuestión ahora bien me llama poderosamente la atención que solo dos semanas después de aprobar esta medida en esta cámara usted venga nuevamente con esta interrogación sobre una decisión ya tomada y me pregunto también qué es lo que pretende usted y creo que

entre unos y otros utilizando la demagogia cortoplacista el confusionismo existente entre lo que es el aforamiento y la impunidad o que utilice el populismo no sé si a usted le sobran los argumentos pero estos son los argumentos que he utilizado siempre y en relación a la pregunta sobre don juan carlos primero

de inviolabilidad el rey don juan carlos primero no es rey

el rey goza de inviolabilidad y lo que hemos criticado desde el partido nacionalista vasco

es también el procedimiento que se está siguiendo o que se ha seguido hasta ayer mismo para dotar de aforamiento a personas que no tienen ninguna responsabilidad pública

sí gracias señor lehendakari me preguntaba qué es lo que pretendía nosotros lo que pretendemos es suprimir todos los aforamientos existentes y evidentemente usted recuerda que aquí

una determinada iniciativa ante la cual ustedes se abstuvieron y votaron en contra de instar al gobierno vasco y al gobierno de españa suprimir todos los aforamientos con lo cual queremos saber si efectivamente usted considera que estos aforamientos deben mantenerse o deben reducirse o deben suprimirse totalmente nosotros pensamos que deben suprimirse en españa hay más de diez mil aforados en euskadi hay más de cuatrocientos aforados hay uno en italia hay uno en francia hay diez en alemania hay cero en reino unido hay cero y en estados unidos hay cero

garantizar que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley nosotros evidentemente pensamos que sí le doy las razones porque efectivamente todos los ciudadanos debemos ser ante la ley porque todos los ciudadanos debemos recibir el mismo trato porque el aforamiento supone una excepción al principio de igualdad una diferenciación

evidente porque a los aforados les juzga o nos juzga determinados tribunales el tribunal supremo o el tribunal superior de justicia que son aquellos tribunales que están efectivamente

pueden obtener estos aforados determinado trato de favor y evidentemente es una diferenciación de trato de unos ciudadanos

y además el aforamiento retrasa el procedimiento y provoca disfunciones y algo que es ciertamente importante una sensación en la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos efectivamente el aforamiento tiene mucho que ver con la impunidad y tiene

con la corrupción es un privilegio es un anacronismo y debe ser suprimido

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro yo le agradecería como agradecería en todo caso que hacemos referencia a comparaciones con otros ámbitos ajenos al nuestro que los hagamos con todo rigor porque

causas de aforamiento diferentes pero también habría que conocer todas las circunstancias y las condiciones en las que se rigen también los sistemas políticos en relación a las personas

aforados se ha olvidado usted de policías de jueces

insisto no vamos a caer en la precipitación ni en la demagogia cortoplacista ni en el populismo

de una semana para otra es necesario un análisis de las causas y de los efectos de una medida que afecta a todo el sistema judicial a la forma de instrucción judicial

de supresión total del aforamiento requiere modificar la constitución el estatuto de autonomía y varias leyes más algo que no se hace evidentemente

ahora bien esta condición supone también una limitación para el propio aforado y para todas las personas procesadas en la misma causa porque pierden el derecho constitucional a la revisión del caso no cabe segunda instancia

del régimen de garantías de los cargos públicos y sus límites en los términos aquí aprobados eskerrik asko lehendakari jauna

sí muchas gracias presidenta en primer lugar quiero agradecer muy sinceramente al resto de grupos parlamentarios de la oposición que han decidido

al gobierno vasco y en concreto en la denuncia de estos hechos relacionados con la vulneración flagrante y evidente de la ley de publicidad

más sincero agradecimiento no son tres casos ya no son tres casos

que han intervenido hablaban de tres casos son ya al menos cinco y podrían ser muchos más vamos a hacer un pequeño repaso de los acontecimientos lo cierto es que tras el primer escándalo conocido

el de la publicidad planteada por el departamento de educación en relación

se ha venido repitiendo varias veces y en varios departamentos del gobierno vasco lo que significa que en nuestra opinión lo que ha habido es una estrategia

y financiar al grupo de comunicación amigo y afín ideológicamente es decir al grupo noticias hay digamos por lo tanto una estrategia del gobierno vasco para en nuestra opinión financiar ilegalemente a

del partido nacionalista vasco y luego hablaremos de las consecuencias que esto debe tener porque evidentemente esto es algo muy serio y todo ello en fin se ha sabido gracias a la labor de control que ha ejercido este grupo

y democracia estamos hablando ya de cinco casos detectados por eso la interpelación iba dirigida al lehendakari estamos hablando ya de varios

involucrados en estas ilegalidades no estamos hablando ya solo del departamento de educación o del departamento de salud sino que habría

que estarían implicados y además estamos convencidos que ha habido

y que esta práctica no ha comenzado a finales de dos mil trece como hemos podido comprobar pero centrándonos en estos casos detectados hasta ahora tenemos publicidad pagada por el gobierno vasco en los medios del grupo noticias noticias de gipuzkoa noticias de álava y onda vasca

afines al nacionalismo gobernante acríticos con sus políticas y que hacen seguidismo de los criterios del partido nacionalista vasco por eso ustedes financiarlos ilegalmente no tanto para que hablen bien de ustedes porque esto ya lo hacen sino yo creo que el objetivo final es financiarlos ilegalmente quizás para que puedan cuadrar las cuentas insertar publicidad pagada para aclararnos

normal en muchos casos obligada por la ley por ejemplo en el caso de las expropiaciones

para informar a los ciudadanos de servicios o campañas de concienciación podríamos estar hablando de campañas de seguridad vial fechas de matriculaciones en los colegios

esto es perfectamente legal lo que no es lícito y lo prohíbe expresamente la ley es pagar por criticar las acciones de otras instituciones

y sin embargo la consejera de educación hace dos semanas en la comisión de educación llegó a disculparse y llegó a decir que esto no iba a volver a ocurrir y sin embargo el portavoz del gobierno vasco dice que todo ha sido perfectamente legal y que no hay ningún problema

y lo prohíbe expresamente la ley es introducir campañas o pagar por informaciones que no están perfectamente identificadas como tales

reportaje debate o programa está pagado con dinero público de los departamentos del gobierno vasco esto es una ilegalidad no se puede hacer y esto es lo que ha ocurrido en estos últimos meses que nosotros hemos detectado tras el caso del departamento de educación en relación a la lomce que ya se ha debatido nos hemos encontrado con otra campaña del departamento de salud que ha pagado catorce mil quinientos veinte euros más iva en los meses de octubre y noviembre

del grupo noticias un escándalo que el gobierno haya pagado por unos reportajes de autobombo que no se identifican como tales

información pagada por el gobierno vasco para que hable bien ese grupo del gobierno vasco que tienen la apariencia de reportajes normales como los que se pueden leer en cualquier página pero que efectivamente es publicidad

al gobierno vasco autobombo propaganda no es de recibo que el gobierno pague en unos medios por informaciones similares a las aparecidas en el resto de periódicos porque salud ha pagado al grupo noticias por informar de la ampliación de la campaña de la gripe por ejemplo es una vergüenza que se pague por entrevistar al director

o al jefe de programas de salud pública se paga para que se les entrevisten

que eso es publicidad y propaganda esto es lo que se ha hecho el consejero no nos quiso responder a esto no nos quiso adjuntar esa información pero hemos llegado a ella este es el segundo caso detectado y denunciado públicamente por upyd

porque ya era el segundo caso lo que significaba que ya no era cosa de una sola consejera que se había despistado o que ignoraba la ley y que incluso pidió disculpas en comisión

quizás de alguna estrategia del gobierno para financiar de forma ilegal

y al partido que lo sustenta de una estrategia del gobierno para mejorar su imagen y sus políticas entre su propio electorado son preguntas que espero que me conteste el lehendakari pero el caso se agrava a medida que siguen llegando respuestas a las peticiones de información realizadas por upyd

referido a publicidad y reportajes contratados por osalan y lo que es intolerable es que la propia directora de osalan firme una resolución aceptando la propuesta económica de la editorial iparraguirre sa deia por catorce mil quinientos euros más iva en el que se incluye

que curiosamente es una entrevista de autobombo a la propia señora directora de osalan una ilegalidad evidente el colmo de la desfachatez firmar el contrato en el que se incluye que entrevisten a doble página por supuesto como en los caso anteriores en ningún lado figura que esa falsa entrevista periodística haya sido pagada con dinero público esta entrevista le ha costado a todos los ciudadanos vascos tres punto cinco mil euros esto es una burda manipulación de la opinión pública se engaña a los lectores ya que se les ofrece una entrevista sin informarles de que es pagada que es autobombo que en realidad en un publirreportaje

en fin en su departamento también ha incurrido en esta misma práctica su departamento ha incurrido también en esta misma práctica en este caso estamos hablando de un contrato con euskomedia sl onda vasca por valor de once mil setecientos noventa y cinco coma cinco euros sí señor lehendakari

las grabaciones de los programas emitidos por esta emisora hasta ahora y en ninguno de ellos repito en ninguno de ellos se cita o se hace la más mínima alusión

subvencionados o patrocinados por el gobierno vasco son programas sobre las euskal etxea y sobre vascos que viven en otros países de nuevo unos programas que son

interés pero no existe ni la más mínima mención a que ese espacio radiofónico está pagado por lehendakaritza es decir con dinero de nuestros

y el último caso que hemos detectado hasta ahora corresponde a otra serie de espacios radiofónicos emitidos también por onda vasca de una hora de duración consistente en entrevistas a personas de destacada trayectoria en el ámbito cultural según se dice por la que se ha pagado once mil seiscientos dieciséis euros

vuelve a vulnerar la ley de publicidad al ocultar que está pagando unos espacios en un medio de comunicación sin que se cite en los mismos en ningún momento que se produce esta

cinco casos lehendakari cinco casos que hayamos podido detectar de incumplimiento de la ley de publicidad se ha ocultado intencionadamente que se trataba de publicidad pagada

se ha estado financiando con dinero público a un determinado grupo de comunicación amigo suyo se ha vulnerado claramente la ley en fin

pregunta usted sobre la publicidad ilegal insertada por el departamento de salud

de la historia pero me ha preguntado usted por la publicidad ilegal insertada por el departamento de salud

yo voy a intentar responderle a las diferentes cuestiones que debía haber mencionado en primer lugar ha aludido usted a que se ha ocultado información

respecto a una solicitud de información documentada relativa a un contrato menor para la elaboración de diversos reportajes

ese es el expediente permítame que le diga a estas alturas nos tiene usted ya muy acostumbrados a las acusaciones de fraude estafa trampa etcétera

en cada pleno de control pero su único objetivo es ocupar espacios parlamentarios después de su interpelación he vuelto a revisar y analizar la respuesta que desde el departamento de salud se remitió atendiendo a su solicitud y hemos comprobado que le hemos facilitado la fecha de emisión de la información la identificación del medio de comunicación el título del contenido de la comunicación el coste económico

a dicho expediente es decir le hemos facilitado todo lo que usted pidió señor maneiro entiende usted que esto es ocultar información mire ocultar información según el diccionario de la real academia de la lengua española es esconder tapar disfrazar

y en el caso que nos ocupa no le hemos ocultado a usted nada

según usted realizó la solicitud se le facilitó toda la información absolutamente

informazio zehatza ematea da eta ez kontrakoa me habla usted de que no se le facilitaron las copias en papel de los reportajes

no teníamos ninguna obligación de facilitárselas fundamentalmente porque ni siquiera las ha pedido y porque con la información enviada podía usted perfectamente

de que hemos supuesto demasiado de todas formas permítame que se lo diga sorprende que un parlamentario le pida fotocopias al gobierno fotocopias de artículos deperiódicos de los que usted dispone título medio de comunicación y fecha de publicación igual confunde usted

con su comodidad y diligencia como parlamentario o la de sus asesores y asesoras no se ha ocultado nada ha tenido usted pleno acceso a la información solicitada

le permite conocer perfectamente los mecanismos para presentar una queja ante el órgano competente en caso de que considere que sus derechos como parlamentario se han visto vulnerados por parte del gobierno pero igual el problema radica

a quien corresponde busca un discurso para la galería en segundo lugar ha aludido usted a que la comunicación realizada contraviene la ley seis barra dos mil diez de publicidad y comunicació institucional de euskadi en concreto ha hecho referencia al artículo

una campaña institucional de comunicación es aquella que utilizando formas de comunicación distintas de las estrictamente publicitarias

enunciados en el artículo dos administración general institucional de la comunidad autónoma del país vasco parlamento vasco

etcétera para difundir un mensaje u objetivo común a una pluralidad de personas destinatarias omite en su discurso señor maneiro que la citada ley distingue

y campañas institucionales de comunicación y en el caso que nos ocupa como se puede deducir de la información que le hemos facilitado

de comunicación y no de publicidad estamos hablando concretamente de tres artículos informativos sobre la importancia de la vacunación antigripal centrados en su consecuencias en la salud especialmente en las personas mayores

artículo informativos de contenido científico y divulgativo incluyendo como usted ha reflejado

al técnico responsable de la campaña un funcionario no nombrado por este gobierno y otro artículo

en concreto sobre su apertura su organización y funcionamiento un artículo

artículos de información no de publicidad por lo que no se ha incumplido dicho normativo no se ha pagado por criticar a nadie y sabemos señor maneiro que de la información enviada así se desprende pero tiene usted mucho más interés en la demagogia y en sembrar dudas sobre la rectitud y el trabajo de este gobierno que en lo demás los reportajes informativos

se enmarcan en el formato de campaña institucional de comunicación regulado

y pretenden comunicar actuaciones de relevancia e interés social

no creo que se pueda considerar publicidad con la finalidad de alabar la gestión de este gobierno ni por usted ni por nadie porque no es verdad su única finalidad es informar para mejorar las tasas de vacunación antigripal y velar por la salud de las personas en ninguno de los casos estamos hablando de campañas institucionales de publicidad nuestra obligación como gobierno es prestar servicios

una labor de pedagogía social para que la ciudadanía conozca los servicios públicos y para concienciar sobre la importancia de la salud no es ni propaganda ni publicidad queremos que la gente se vacune y le informamos para que lo haga queremos que la gente conozca el hospital de gernika lumo y lo utilice a esto le llama usted propaganda a esto le llama usted autobombo

le recuerdo que estamos como usted muy bien ha mencionado de un importe de un contrato menor

respecto a cuatro artículos de prensa tres de ellos el mismo día uno por territorio histórico sobre el mismo tema

difícilmente va a salir un medio de comunicación con ese dinero a mayor abundamiento permítame que le diga que analizados el conjunto de patrocinios publirreportajes campaña inserciones acciones informativas etcétera

comparado esto con lo ocurrido en ejercicios anteriores

ni en su distribución cuestiones escandalosas en esta legislatura le voy a poner un ejemplo

cuatrocientos treinta y uno mil ochocientos cuarenta y cinco euros el actual departamento de salud el año pasado

nadie protestó no creo que usted tampoco

el artículo nueve viene a determinar y a regular las contrataciones externas estableciendo al respecto

ley tres barra dos mil once por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público en este sentido habida cuenta de que la interpelación que ha hecho usted hoy aquí nos hayamos ante un contrato menor la tramitación del expediente se ha realizado cumpliendo todos los requisitos

lo que implica que los recursos económicos no han sido objeto de una inadecuada contratación administrativa por todo lo expuesto

como las por usted expuestas señor maneiro al contrario no se ha ocultado información no se ha incumplido

la contratación se ha realizado cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa de contratación de la administración pública no estamos financiando

sí gracias presidenta lo cierto es que estamos hablando de cuatro departamentos del gobierno vasco involucrados estamos hablando de cinco casos que han vulnerado y vulneran la ley de publicidad no entiendo yo por qué me tiene que responder el consejero de salud porque estamos hablando

ustedes insisten en que todo es perfectamente legal por favor que la consejera de educación explique por qué en la última comisión de educación dijo que esto no
iba a volver a repetirse que ella maneiro jauna aurreko txandan utzi dizut

ez gainerako gaietaz bestela interpelazioa berriro diot beste modu batera egin hobeto egin no la interpelación no se puede hacer mejor porque está perfectamente hecha

le quiero recordar al consejero de salud que la propia consejera de educación en relación a un hecho semejante en la última comisión de educación dijo que esto no podía volver a repetirse y por lo tanto estamos hablando de cuatro departamentos del gobierno vasco involucrados en

claras ilegalidades no desvíe usted la atención sobre si nos ha trasladado toda la información o no no se preocupe usted que nosotros vamos a tener toda la información y la estamos recopilando efectivamente y no

y vamos a lograr tener toda la información adicional de ese departamento y de otros departamentos porque tenemos un buen número de preguntas y de solicitudes de información documentada

y las denuncias políticas que consideramos esto no es demagogia

esto es un asunto lo suficientemente serio como para que ustedes vengan aquí y expliquen qué es lo que están haciendo en lugar de

haciendo yo le recuerdo qué es lo que dice la ley y las prohibiciones en relación a las campañas institucionales el artículo cinco

manifiestamente menoscaben obstaculicen o perturben las políticas públicas o cualquier actuación legítima realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias esto tiene que ver con la campaña realizada por el departamento de educación y lo que dice el artículo cinco punto cuatro

que no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la administración o entidad promotora contratante y aquí estamos hablando de información que realmente se presenta como si fuera información y no es información sino que es una campaña pagada por el gobierno vasco para que entreviste

determinada información a los ciudadanos por lo tanto engañan a la población plantean como noticias lo que es publicidad y no se identifica como tal deben hacer por lo tanto todo lo posible evidentemente para recuperar dinero en nuestra opinión ha habido un incumplimiento de la ley en nuestra opinión ha habido una financiación ilegal por parte del gobierno vasco a determinados medios afines en nuestra opinión podríamos estar hablando de malversación de fondos públicos y en nuestra opinión podríamos estar hablando de prevaricación como hay dudas o ustedes tienen dudas sobre qué es lo que va hacer upyd vamos a tratar de que sea justicia la que dirime esta cuestión vamos a poner este asunto en manos de la justicia para que efectivamente se compruebe si hay delito o no nosotros pensamos que sí nosotros pensamos que ha habido una ilegalidad manifiesta de la ley

pensamos que ha habido malversación de fondos y pensamos que ha habido financiación ilegal de un determinado grupo de noticias amigo del gobierno vasco por lo tanto

esta documentación en manos de la justicia que lo dirima la justicia seguiremos denunciando estos hechos políticamente con la correspondiente moción tenemos ya registrada una proposición no de ley

en fin haya por el mes de octubre si no antes y en todo caso

vamos a entregar a la justicia toda la información de la que disponemos porque en nuestra opinión aquí existe delito y por lo tanto se debe conocer qué es exactamente lo que ha ocurrido y los ciudadanos deben saber qué es exactamente lo que ha hecho el gobierno y qué es

el gobierno y cómo ha vulnerado por lo tanto la legalidad vigente que lo dirima la justicia eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

de este parlamento y del estado de derecho por lo tanto las tiene pero usted ha interpelado sobre la publicidad ilegal insertada por el departamento de salud

estamos hablando de la publicidad ilegal del departamento de salud hoy aquí una vez más demuestra que pide usted explicaciones y le dan igual las respuestas

cumplimos la ley no es de otra manera la ley de publicidad

de que este gobierno acepta las críticas y acepta también que es preciso poner todos los medios a nuestro alcance para evitar situaciones que pueden inducir a error hobetzeko gure esku dagoena

egunero egunero hobetzen saiatzen gara no es cierto que exista y se lo voy a decir claramente

de apoyo a determinados medios de comunicación es falso confunde usted comunicación con publicidad son dos cosas diferentes este gobierno y este departamento apuesta por la transparencia informativa

y también apuesta por un buen uso de los recursos públicos lo hemos demostrado

y apostamos de una comunicación de nuestras instituciones públicas que garantice una información objetiva ordenada y orientada a la difusión de mensajes que den a conocer los servicios que prestamos

la ley de publicidad y comunicación institucional de euskadi contempla los requisitos que deben cumplir las campañas de comunicación institucional y también contempla los mecanismos

así en el artículo ocho señala se podrá solicitar la suspensión inmediata o la rectificación de aquellas campañas que puedan incumplir los preceptos de esta ley la solicitud de cesación o rectificación se presentará ante el órgano

de las administraciones públicas sujetas a esta ley es decir en este caso la comisión interdepartamental de publicidad

no le ha interesado nada por lo tanto existe una norma y esa propia norma contempla el procedimiento a seguir

que se ha vulnerado su cumplimiento usted que tanto apela a la ley utilice los procedimientos de la misma sea coherente legea hor dago eta guztiontzat

ocultación de información no se ha incumplido la ley seis barra dos mil diez de publicidad y comunicación institucional de euskadi no estamos financiando a nadie la contratación se ha realizado cumpliendo con los requisitos establecidos

gracias me confirma la presidenta que la interpelación va dirigida al lehendakari pero que me puede

en este caso el consejero de salud pero en todo caso lo importante es el contenido de la interpelación

que hace ya dos o tres meses en un pleno de control hacíamos una pregunta oral

en la que empezábamos diciendo queríamos preguntarle al lehendakari si considera que el tribunal vasco de cuentas públicas está politizado

si considera que el lehendakari está politizado qué medidas el gobierno vasco estaría dispuesto o cuáles medidas consideraría el gobierno vasco que pudieran ser positivas para avanzar en la despolitización y por lo tanto en una mayor profesionalización

es decir le decía yo al lehendakari si existe el problema y en caso de que exista este problema cuáles son las medidas que usted considera que podríamos tomar y decía quizás entre todos el señor gatzagaetxebarria una respuesta técnica digamos y yo en el turno de réplica le decía quizás habría que buscar la fórmula para que los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas sean elegidos por los partidos políticos porque esto incide después en el trabajo que realizará este tribunal vasco de cuentas públicas a la hora de analizar

gobiernos etcétera y yo le decía si los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas son elegidos por los partidos políticos puede ocurrir y es evidente que ha ocurrido

sea servir a los intereses de esos partidos políticos que los eligieron lo cierto decía yo es que ha habido varios informes en los últimos tiempos que han sido

los informes originales preparados por el ponente para beneficiar los intereses de determinados partidos políticos me refiero en concreto decía a un informe relativo a lanbide y un informe relativo a aic para beneficiar en este caso los intereses del partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi y decía yo podríamos asistir o estar asistiendo a una especie de pacto entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi para taparse

nuestra obligación es atender este grave problema despolitizar en lo que podamos el tribunal vasco de cuentas públicas y avanzar en su profesionalización y decía puede ocurrir en los próximos meses en relación por ejemplo al caso epsilon

una especie de pacto entre diferentes partidos políticos para reducir el informe que

y en ese momento un servidor era interrumpido por determinados parlamentarios socialistas y entonces yo les decía relájense ustedes no se pongan nerviosos relájense y no se pongan nerviosos y lo cierto es que prácticamente no pude terminar

lo que se ponía de manifiesto es nuestra preocupación ante la politización existente en el tribunal vasco de cuentas públicas y qué medidas podríamos impulsar

los propios grupos parlamentarios para avanzar en su despolitización para avanzar en su profesionalización y asegurar que el trabajo que realice sea el mejor posible que es al fin y al cabo lo que nosotros pretendemos en fin basta leer los diferentes medios de comunicación en las últimas semanas para

para profesionalizarlo leo distintas informaciones churiaque esquiva la moción de reprobación de pnv

suspendido el pleno del tribunal vasco de cuentas públicas tras la petición de aplazamiento de los cinco consejeros críticos con la actuación de churiaque

obligado ir a plenos y que no pueden pedir aplazamientos sin

los críticos amenazan ahora con bloquear el tribunal de cuentas

plantan a churiaque en señal de protesta pnv y pse boicotean el pleno del tribunal vasco de cuentas públicas al no poder reprobar

no están hablando ya de determinados consejeros que fueron elegidos por determinados partidos políticos sino que incluso ya se habla que determinados partidos políticos están dentro del tribunal vasco de cuentas públicas y nosotros nos oponemos absolutamente a esto la negativa de churiaque a rectificar bloquea el funcionamiento del tribunal vasco de cuentas públicas

la crítica a los gobiernos de pnv y pse en el caso de epsilon en fin todo esto yo creo que evidentemente demuestra que hay que modificar el funcionamiento interno y la forma de elegir a los consejeros

reflexionemos sobre esto y pensemos entre todos qué mecanismos se pueden impulsar para poner orden a esta cuestión porque los últimos acontecimientos ciertamente

reflexiones y sus aportaciones muy medidas todas algo que le caracteriza desde que usted es consejero antes no tanto pero ahora sí

está cumpliendo su labor el tribunal vasco de cuentas públicas está cumpliendo correctamente la labor que debería cumplir podría hacer algo este gobierno para tratar de que el tribunal vasco de cuentas públicas funcione mejor a como está funcionando en los últimos tiempos

el parlamento vasco observar qué es lo que está ocurriendo en el tribunal vasco de cuentas públicas y tratar de impulsar determinadas medidas para corregirlo para despolitizarlo

surge de este parlamento y según usted esto es lo que confiere a cada uno de los consejeros del tribunal vasco de cuentas públicas legitimidad democrática

es que los consejeros del tribunal vasco de cuentas públicas en fin o algunos de ellos respondan a los intereses de los partidos políticos que los eligieron esto es lo que en ningún caso puede ser y esto es lo que hay que corregir

pero esto hay que corregir no puede ser que los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas estén dentro de ese tribunal ya digo o algunos miembros

si el tribunal funciona así no tiene en nuestra opinión ningún sentido o se cambia esto o se cierra pero nosotros somos partidarios de cambiarlo de despolitizarlo de sacar del tribunal los intereses de determinados partidos políticos

instituciones y esto hay que corregirlo rápidamente y cuanto antes porque si no el desprestigio del tribunal vasco de cuentas públicas va a ir creciendo

está todo bajo sospecha nada tiene ya prestigio y por lo tanto o nos ponemos las pilas y cambiamos esas cosas o si no

el populismo y el discurso de la antipolítica que quizás puede empezar a ocurrir está ocurriendo ya en españa y esto es lo que hay que hacer reformar las instituciones para modernizarlas y hacer que funcionen bien en fin el señor

adaptación de la normativa europea que afecta a los organismos de control de la unión europea modernización de la ley del tribunal vasco de cuentas públicas especialmente en relación

tener en cuenta que hoy en día los criterios de confidencialidad y de reserva no tienen sentido la confidencialidad y reserva lleva a que la modificación del trabajo de los auditores se hace por consenso y no por criterios de profesionalidad y técnicos todo esto lo decía el presidente del tribunal vasco de cuentas públicas por lo menos habrá que escucharle para

en la ley decía que es necesario que las actuaciones de los órganos colegiados se hagan en actas con propuestas y motivaciones por escrito y públicas

lo que ha hecho la autoridad fiscal independiente por ejemplo televisar plenos para que se vea quién es independiente y quién está bajo la influencia de terceros lo que hay que corregir es que los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas no pueden estar ahí dentro para defender los intereses de unos o de otros partidos políticos esto es lo que hay que corregir y esto es lo que nosotros exigimos o planteamos y vamos a plantear a través de una moción al resto de grupos

ya digo en algún caso esta situación puede beneficiar a unos en otra situación puede beneficiar a otros y nosotros somos partidarios de que las instituciones funciones bien y en este caso concreto de que

el tribunal vasco de cuentas públicas los ciudadanos están observando qué es lo que hacemos y qué es lo que está ocurriendo las instituciones tienen cada vez menos prestigio se está hundiendo el sistema en muchos aspectos reformarlo desde dentro del sistema hay que reformar esta cuestión y otras muchas y es lo que nosotros vamos a proponer a través de la moción correspondiente

emocional porque cada vez son más frecuentes las situaciones de ansiedad estrés y depresiones entre las personas familias que se encuentran en una situación desesperada y no ven la luz

pero también deterioro físico derivado de una mala alimentación y por falta de una temperatura idónea en sus hogares por ejemplo situación que derivaría en la pobreza energética de la que tanto se habla últimamente en este parlamento y para la que parece que ninguno de ustedes tiene solución

osasunean diferentes estudios recientes ponen de manifiesto

en riesgo de pobreza tienen más posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares de hecho se conocen ya como los niños y las niñas de la crisis porque los problemas que sufren ahora tendrán una influencia directa en su edad adulta por no hablar de las personas que abandonan un tratamiento médico o dejan de comprar un medicamento porque necesitan

y nos preguntamos dónde queda el plan de salud dos mil trece dos mil veinte si efectivamente es un plan transversal

que están en una situación derivada de esta crisis están teniendo en cuenta estos datos para poner en marcha medidas urgentes que acaben con esta situación porque en araba bizkaia y gipuzkoa hay personas que tienen mala salud a consecuencia de su situación económica y aunque al señor urkullu también le cueste creerlo también hay personas que pasan hambre que buscan alimento en la basura

ciudades es fácil comprobarlo de primera mano la situación de pobreza que sufren vascos y vascas y por desgracia últimamente parece que son más vascas que vascos

que evidencia que las mujeres madres con hijos e hijas a su cargo familias monoparentales viudas son cada vez más pobres la feminización de la pobreza es más evidente cada vez más clara

también en este ámbito implantando medidas concretas y volvemos a preguntarnos dónde queda el sexto plan de igualdad también es un plan transversal

qué medidas concretas se plantean también desde este departamento para acabar con esta situación eh bilduk argi du jaurlaritzak lan asko daukala egiteko egoera honekin

la carga fiscal sigue estando centrada en la clase trabajadora las grandes fortunas y las personas más ricas tienen a su disposición

en definitiva para no contribuir de manera solidaria a nuestra sociedad algunos siguen afirmando como la nueva reforma fiscal que el partido popular demuestra

y a las personas que depende ustedes quieren una kutxabank que busque maximizar beneficios renunciando a atender a esas personas

económicamente y que como consecuencia tendrán muchas dificultades para entrar en el propio sistema y obtener crédito o una sencilla cuenta corriente donde cobrar una prestación

espíritu fundacional de las cajas esa caja que todavía hoy en día sigue dejando

erakunde horiek beraiek la realidad

infinitamente mejor que la de comunidades de nuestro entorno

en navarra del cero coma dos en asturias del cero coma uno

del cero coma nueve del conjunto del presupuesto que se destina en todo el estado español a ayudar a personas en situaciones de necesidad mediante las rentas de garantía y las ayudas de emergencia social el cuarenta y uno coma seis por ciento corresponde a euskadi estos datos ya los hemos ofrecido en esta cámara pero parece que no importan no reconocer todo esto hacer creer que no se hace nada como hace esta interpelación hacer creer que las instituciones no se preocupan

y en consecuencia lo pone en peligro y esto cada vez nos preocupa más cada vez nos preocupa más porque además de esa postura

tampoco faltan voces que no comparten que las administraciones dediquemos los recursos que dedicamos a este ejercicio solidario a garantizar en definitiva

hay quien no comparte las políticas destinadas a atender las situaciones de necesidad de una parte de la sociedad al menos de algunos colectivos concretos necesitamos créanme un pacto por la legitimidad de nuestro sistema de protección social

entre todos lo estamos poniendo en peligro la confrontación entre estas posiciones y su difusión hace que muchas veces echemos en falta voces que pongan en valor

expresado a través de sus instituciones y de la intervención también de los agentes

y cuando hablo de instituciones y de recursos me refiero al conjunto del país no en exclusiva a nuestro gobierno continúa su justificación con otra serie de afirmaciones que tampoco puedo aceptar como ciertas

salvo una la menor disposición de presupuestos públicos menor disposición y a pesar de eso mantenimiento del gasto mantenimiento de nuestro sistema de protección

por cierto no veo diferencias sustanciales entre lo que hacemos unos y otros cuando se trata de asignar recursos escasos a necesidades crecientes falta de liderazgo recortes precarización del sector público ausencia de estrategias para la inclusión social ausencia de actuaciones públicas para la promoción del empleo son afirmaciones que no podemos aceptar

porque no son ciertas y porque dibujan un escenario falso

sobre las medidas que va a tomar este gobierno para evitar la fractura social como si no hubiéramos tomado ninguna

y va a aplicar las nuevas medidas que ha aprobado para los próximos meses y años en el ámbito de la lucha contra la crisis y el empleo le cito solo algunas

la pcv con el alivio que ello ha supuesto para miles de personas que tenían que esperar meses para recibir un recurso imprescindible

se ha mantenido desde ese servicio y a pesar de la reducción general de recursos el esfuerzo económico por la integración sociolaboral de personas con discapacidad

también se está ultimando el plan de inclusión activa antes llamado plan de lucha contra la pobreza para racionalizar y obtener la mayor eficacia de los recursos disponibles

y en el dos mil catorce para atender a más necesidades aunque no les guste reconocerlo se han subido las aes

para ayudar a las personas que ven reducidos sus recursos nada más iniciar la legislatura aprobamos un primer programa de reactivación del empleo

a través de un programa marco por el empleo y la reactivación económica se ha puesto en marcha con la colaboración de las entidades locales de euskadi un plan de empleo local y comarcal que está llegando ya a miles de personas se incluyen también enestos programas renove de vivienda se han articulado mediante convenios con eudel y con el consejo general del poder judicial protocolos para evitar que personas en situaciones de necesidad sean desahuciadas se han articulado también

para personas que pueden ser desahuciadas se han articulado medidas también desde el departamento de salud al cual usted ha hecho referencia para compensar el copago farmacéutico del gobierno de madrid se han articulado medidas

que es atendida por nuestro sistema de salud está plenamente satisfecha con nuestro sistema de salud

también en nuestra comunidad como siempre porque hemos sido pioneros se ha mantenido la atención sanitaria a una población tan vulnerable como las personas inmigrantes

lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo para evitar las consecuencias de la crisis en las personas más vulnerables y esto es lo que vamos a seguir haciendo

lo pase mal es una prioridad para este gobierno a las personas más débiles es una prioridad para este gobierno y salvaguardar la dignidad de las personas de todas y cada una de ellas es una prioridad para este gobierno

de renta de garantía de ingresos pero también de salud de igualdad de política fiscal de kuxatbank porque estamos convencidas y convencidos

y de fractura social y de cronificación de la pobreza hace falta la implicación de todos los departamentos del gobierno

yo no he dicho que ustedes no hagan nada señor consejero solamente le he dicho lo que creemos que hay que hacer porque para decir lo que ustedes hacen ya están ustedes postura es decirles lo que creemos que tienen que hacer también le he nombrado la rgi

no estamos en los mismos límites en la misma cobertura que en el año dos mil ocho tres años de empadronamiento recorte del siete por ciento propuesta que hemos intentado cambiar en este parlamento y no han querido

en nuestros discursos hace dos semanas lo dijimos se ha incrementado el presupuesto pero también tenemos que decir que no llega

y nos habla de la rgi de que parece que vamos mejor de que son datos objetivos

una persona con hijos a su cargo tres años en desempleo cobrando poco más de cuatrocientos euros al mes

hace siete meses y no ha recibido respuesta existen casos como

con su planteamiento entonces deduzco que si esa persona viene a exponernos su problema tenemos que responderle mire no se preocupe usted porque si usted hubiera nacido en cuenca en badajoz o en almendralejo estaría bastante peor de lo que está aquí

no negamos que tengamos un buen sistema pero que estamos en una situación que hay que poner medidas ya sabe lo que ocurre cuando una persona repite sus dogmas una y otra vez que se los termina creyendo pero eso ni cambia ni oculta la realidad

en la tercera pregunta le hemos escuchado al señor lehendakari hablar

de lo que va a ocurrir en el futuro aurrikuspenak beno ba

emaitzak le voy a enseñar una portada berria plater hutsak

seguramente que cuando decidieron poner esta portada en este periódico no fue porque el rojo quedaba muy bien con el blanco y el negro es que esta es la realidad

un día sí y otro también sabe lo que ocurre en esas comparecencias que décimos gracias por venir ya leeremos sus informes mucho animo

no tenemos que poner soluciones ya porque en la calle nos lo están pidiendo en este parlamento nos lo están pidiendo nos están diciendo

en diez minutos no ha logrado convencerme a ver si en los cinco que le quedan es capaz de que salga de aquí de este pleno hoy con otra idea

mire probablemente es difícil que le convenza porque seguramente las frecuencias no son las mismas y es difícil entendernos

cuando alguien tiene la obsesión por demostrar la inacción del gobierno es difícil es difícil en ese caso demostrar que

el gobierno actúa de la mejor manera posible y es triste ver cómo

recientemente estuve con víctor renes responsable de investigación

y es triste por una parte y no autocomplaciente por otra pero sí legitimador por otra cómo tienen que venir de otros lugares a reconocer que lo que se hace aquí no se hace en ningún lado

que cuidemos mucho lo que estamos haciendo porque socialmente es cada vez más frágil y será responsabilidad nuestra como gobierno

del conjunto de las fuerzas de este parlamento los mensajes que hagamos llegar a la sociedad por eso prefiero quedarme

con su ofrecimiento para seguir desarrollando políticas que desde luego

de antemano acepto pero quiero seguir ofreciendo datos datos sobre la realidad de lo que hacemos en este gobierno el último estudio sobre la pobreza y desigualdades sociales dice que el impacto del sistema de prestaciones hace que las ayudas lleguen al setenta y ocho por ciento de la población con carencias

y en el conjunto del estado el siete por ciento si no llega a más es porque no se cumplen los requisitos como el tiempo de empadronamiento que usted ha citado o otros requisitos

que llegan a esas personas y otros recursos de diputaciones y ayuntamientos solo hay una institución que yo conozca que ha establecido en esta legislatura que ha aumentado el límite de empadronamiento no se la voy a mencionar solo hay una institución que ha aumentado de seis meses a un año

para recibir un tipo de ayudas dice también el estudio que el sistema de garantía de ingresos contribuye junto a otros factores como las pensiones a mantener las tasas de pobreza y exclusión social por debajo de las cifras de la unión europea

el riesgo de pobreza está entre uno y tres puntos por debajo de la media de los quince países más ricos de europa tenemos el deber de cuidar esto

el vigente programa marco de empleo y reactivación económica dos mil catorce dos mil dieciséis tiene una previsión de seis mil cuatrocientos setenta y cinco millónes de euro

no será suficiente pero eso está llegando a día de hoy a miles de personas a día de hoy está llegando a miles de personas que gracias a ese plan que gracias a esos programas

que se están ejecutando y que por lo tanto tienen efectos esta es una apuesta de futuro cuyos antecedentes dan muestra de su impacto el año pasado el plan de empleo facilitó la creación de más de diez mil puestos de trabajo no llegamos a los doce mil pretendidos pero más de diez mil

están otros planes de actuación como los planes locales que han pasado de cinco millónes a veinte millónes de euros en total los proyectos presentados por las entidades de los tres territorios

finalmente fuera del ámbito de actuación de este consejero pero como he citado anteriormente le diré que las ayudas

suponen una inversión de dieciocho millónes de euros a los que hay que sumar otros tres para atender a grupos de inmigrantes que en algunas comunidades no tienen cobertura alguna
no es que repita mis dogmas sino que creo en mis dogmas y por eso los repito eskerrik asko eskerrik asko aburto jauna

emakunde eta arartekoaren parte hartzearekin sabemos que como gobierno están trabajando en esta clave a través del espacio interinstitucional reconocemos su labor señor lehendakari pero le pedimos que vayan mucho más allá que den pasos valientes que muestren la honestidad de su compromiso empezando por exigir a los dos alcaldes de irun y hondarribi el respeto por el alarde igualitario y la compañía recibiéndola con los mismos honores con los que cada año se recibe al alarde discriminatorio pero vamos más allá como miembro del partido nacionalista vasco le solicitamos que exija a aitor kerejeta que de una vez por todas

a la compañía jaizkibel el próximo mes de septiembre y que se sume públicamente al proceso de resolución que se articule durante los próximos meses desde un espacio interinstitucional por cierto cabe recordar que este año las juventudes socialistas premiarán el alarde mixto

la celebración de los alardes igualitarios es un objetivo de este gobierno señora urrea es una aspiración que venimos defendiendo y apoyando desde legislaturas anteriores las instituciones municipales su máximo representante el alcalde tiene la responsabilidad de gestionar

la convivencia de su ciudadanía la cuestión del alarde sabe usted que ha generado enfrentamientos que ha estado sujeta a procesos judiciales durante varias décadas ya nosotros vamos a seguir contribuyendo a buscar soluciones de consenso y lo estamos haciendo como usted ha indicado en el seno de la comisión interinstitucional con la diputación de gipuzkoa el ararteko emakunde y el conjunto de nuestro gobierno y no es una cuestión esta

en esta época del año sino que es una cuestión que está permanentemente en la agenda

señor urkullu los derechos no se negocian no se votan

lucha para protegerlos para no perderlos y de eso las mujeres sabemos un rato no ponemos en duda y como se lo hemos dicho en la primera intervención no ponemos en duda

que están llevando a cabo pero consideramos que es momento de ir más allá de ir más allá de visibilizar ese trabajo que efectivamente a nivel institucional se está llevando a cabo para que de una vez por todas los derechos para todas las personas en irun sean reconocidos los alardes tradicionales no

constarán como uno de los puntos más vergonzosos en la historia de euskal herria

y por un alarde igualitario y público es el único lugar en el que se defiende a quienes quebrantan la ley y se castiga a sus defensoras y defensores señor urkullu comprométase hoy aquí

el éxito de las políticas públicas necesita comprensión y colaboración de la ciudadanía la cultura de la igualdad

en concepto de conquista yo quiero insistir en que la cultura de la igualdad se ha ido abriendo paso y se ha ido abriendo paso desde la convicción y no desde la imposición y el compromiso y la determinación de este gobierno con la igualdad de mujeres y hombres es firme

igualdad este es el método de trabajo que proponemos también en relación a los alardes soluciones desde el consenso insisto podrá costarnos más tiempo pero tenemos que conseguir que desde la convicción avance el cambio cultural que representa la igualdad las instituciones municipales tienen la responsabilidad de gestionar

tanto en los días señalados como el resto del año lo deben hacer sin olvidar su obligación de contribuir a la consecución del derecho a la plena ciudadanía de las mujeres

llanos anderea zurea da hitza gracias de nuevo señora presidenta

en ella se refería a la existencia de un plan a y en el caso de que ese no obtuviera respuesta satisfactoria por parte del gobierno de españa hablaba de que había otras vías asimismo

en esa misma línea expresaba su apuesta por el diálogo y el acuerdo pero que en caso contrario llevará adelante su propuesta con

mucho al señor mas indicaba en la misma entrevista que apostaba por explorar el diálogo y el acuerdo pero que cuando no lo haya hablaremos de otras cosas sus palabras señor urkullu se mueven en esa ambigüedad calculada en la que usted se maneja como pez en el agua pero creemos que es hora de que se posicione de manera clara y nítida

la incertidumbre no es buena consejera y mucho menos en los tiempos que corren la ciudadanía vasca tiene derecho a demandar y usted la obligación de responder a sus demandas y una de ellas y no de carácter menor es conocer hacia dónde nos quiere llevar y cuál es nosotros como partido político intuimos cuáles son sus planteamientos

pero entendemos que debe ser usted en primera persona y en este foro donde reside la voluntad popular de los vascos donde tiene que responder por ello

queremos conocer cuál es ese plan b para la modificación del actual estatus político y si realmente cree que ofrece garantías de futuro y de mayor bienestar para los vascos

señora llanos no soy yo el que ha hablado de planes ni de plan a ni de plan b

quiero insistirle toda esta cámara sabe que el nuevo estatus

y el que defiendo que debamos conseguir debe ofrecer garantías toda la cámara todo el parlamento sabe que el actual estatus no las ofrece el año noventa y tres

una ley orgánica el actual estatus no ofrece garantías porque sigue sin cumplirse veintiuno años de aquel informe

o todos obviamente no queremos todos lo mismo por eso es el momento de los principios y el primero que también compartimos es

así lo ha formulado también mi grupo parlamentario el grupo nacionalistas vascos y el partido nacionalista vasco este nuevo estatus tendrá que ser refrendado por la ciudadanía y respetado y cuando hablo de llegar hasta el final

a un acuerdo pactado aquí en el parlamento y ratificado por la sociedad vasca necesitará por lo tanto unas garantías de cumplimiento futuro

ni ha tenido ni tiene aquí está el origen del problema político y aquí tiene que estar el origen de la solución señora llanos eskerrik asko

previsible en sus respuestas y su manifiesta ambigüedad empieza a ser un monólogo interminable pero como también usted suele decir aquí nos conocemos todos y más allá de esas moderadas tonalidades acústicas que usted suele utilizar tiene una hoja de ruta prefijada de antemano

y esa hoja de ruta lo que persigue es modificar el actual marco jurídico ustedes no pretenden a pesar

ustedes lo que persiguen y lo ha dicho es dar un nuevo estatus político y no es lo mismo evidentemente modificar el estatuto que modificar el estatus político ustedes no pretenden

porque entienden el acuerdo y el diálogo de forma unilateral es decir acuerdo y diálogo para que el gobierno de españa acepte lo que yo proponga para que los demás aceptemos lo que ustedes propongan ustedes utilizan palabras que aparentan moderación sensatez

pero que no lo son y lo digo porque ustedes entienden el acuerdo el diálogo y la pluralidad como sinónimo de adhesión inquebrantable a sus planteamientos

qué van a hacer ustedes ahora he de reconocer que tienen facilidad en manipular el lenguaje en camuflar y en revestir sus verdaderas

pero nosotros no podemos sino mostrar nuestra inquietud y nuestra preocupación por sus apuestas políticas sus aspiraciones generan muchas dudas generan infinidad de incertidumbres su proyecto de ruptura revestido de legalidad supone

en términos económicos y de bienestar para la sociedad vasca su proyecto nos saca de españa nos saca de europa su proyecto pretende encerrarnos en un mundo

eso lo deberían contar a los vascos porque los vascos lo que necesitamos es seguridad y bienestar necesitamos certidumbres

ni con españa ni con europa y usted es el responsable de cubrir esa necesidad eskerrik asko llanos andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea previsible en sus respuestas claro si es que son previsibles las preguntas

previsible en las respuestas evidentemente en las respuestas que

desde el debate de investidura le suena a usted diálogo le suena a usted acuerdo le suena a usted mano tendida

y de tantas otras cuestiones que he puesto sobre la mesa en relación a lo que deberían ser las bases y principios de un acuerdo en el estado

señora llanos mírese por un momento a sí misma y a su grupo a sí misma y a su grupo usted representa y respalda al gobierno español del partido popular usted

desentiende de las actuaciones del presente porque le quiero recordar que el presente día sí y día también el gobierno español está actuando y legislando

se nos acusa de victimismo le voy a decir cuál es el balance de esta legislatura a día de hoy nueve recursos presentados por el gobierno vasco ante el tribunal constitucional doce leyes que se han tenido que remitir a la comisión bilateral estado euskadi

tres conflictos positivos de competencia presentados por el gobierno vasco nueve más doce más dos

veintiséis cuestiones en dieciocho meses de legislatura no salimos del tribunal constitucional nos vemos obligados a una tensión permanente en la comisión bilateral el estatuto punto de encuentro para ustedes no se cumple se aprueban leyes en españa

la bilateralidad no existe sí señora llanos necesitamos un nuevo estatus político con garantías el actual no las tiene y está